batean en los términos que se señalaban en este convenio fueron licitados varios tramos de un total de seis tramos en los

han sido licitados a lo largo del tiempo desde ese dos mil ocho en el que se firmó el convenio hasta hoy han sido licitadas

eskerrik asko una en tiempos de gobierno del lehendakari ibarretxe

del lehendakari lópez en los pliegos en el marco de la normativa vigente en cada momento se incorporaban las prescripciones jurídicas económicas y técnicas

de conformidad con los requisitos que establecía el ordenamiento jurídico vigente tanto es así que se incorporó una cláusula en cuanto al ámbito laboral con el contenido literal siguiente

en materia de legislación laboral y social así como aquellas otras que entran en vigor durante la ejecución del mismo

en el que se citaban las normas reguladoras que regían durante la vigencia del contrato incorporando una cláusula residual que señalaba

de por las normas enumeradas por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel estatal como comunidad autónoma de euskadi y que resulten aplicables en el ámbito de la misma como ustedes bien saben al estar agotado presupuestariamente el convenio señalado

de colaboración suscrito en el dos mil ocho las partes acordamos definir un nuevo marco de colaboración a través de un nuevo convenio para dar continuidad a las obras de la línea tres además tengo que decir que también esta cámara se ha pronunciado ya repetidas veces en la necesidad de dar continuidad a esas obras de la línea tres

en el plazo más breve posible y en concreto tenemos el compromiso de por supuesto de esta cámara y también

tener esas obras en marcha antes de terminar el año dos mil dieciséis pues bien hemos tramitado un nuevo convenio de financiación

de noviembre de dos mil trece ha venido a esta cámara y nos encontramos con que el grupo parlamentario eh bildu propone incorporar en el convenio el compromiso de que los pliegos de licitación de la obra dispongan y serán de aplicación los convenios colectivos sectoriales territoriales

de incorporación de cláusulas sociales en los contratos de obras del sector público foral tengo que decir que esta normativa foral ha sido recurrida tanto por la autoridad vasca de la competencia

por tanto entendemos que esta propuesta es jurídicamente insegura

y por tanto por un sentido mínimo de prudencia y con el objetivo de dotar a la contratación pública cierto de seguridad jurídica no nos parece conveniente trasladar miméticamente al conjunto de las administraciones públicas vascas

por doble partida en el contencioso administrativo además el gobierno entiende entendemos

unas condiciones laborales dignas de seguridad y salud laboral y prevención de riesgos laborales de los trabajadores y trabajadoras que estén siendo empleados o empleadas en la ejecución de las obras o la prestación de los servicios contratados y en particular me referiré o en concreto me referiré a la instrucción seis barra dos mil ocho de dos de junio

en la que el consejo del gobierno aprobó entre otros la incorporación de criterios sociales en los procedimientos de contratación de la administración de la comunidad autónoma y de su sector público

y obliga a los órganos de contratación a respetar lo dispuesto en la misma a la hora de elaborar los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares de los contratos regulados en la legislación de contratos esta instrucción

la incorporación de cláusulas sociales en contratos de obras del sector público foral no limita la incorporación de los criterios sociales en los procedimientos de contratación correspondientes a obras

a otros tipos contractuales por tanto el cumplimiento de la ordenanza laboral y el convenio colectivo correspondiente por parte del adjudicatario para cualquier tipo de contrata

está prevista encajando como es debido en el ordenamiento jurídico y evitando la inseguridad jurídica que pudiera producir la inserción de una cláusula

el pasado veintitrés de mayo esta cámara aprobó una enmienda transaccional firmada por los grupos parlamentarios popular socialista mixto y nacionalistas vascos en la que haciendo un repaso rápido se instaba en primer lugar al gobierno y a la diputación foral de bizkaia garantizar la financiación necesaria para que se pudiera inaugurar la línea tres del metro etxebarri matiko antes de que finalizase

coincidiendo en aquel momento todos los proponentes en que estábamos ante una apuesta estratégica y de futuro incluso ratificada por el partido socialista ya que forma parte del acuerdo presupuestario

se instaba también en segundo lugar a destinar parcialmente el incremento de los recursos públicos derivados de la ampliación del plazo de corrección del déficit público a la partida presupuestaria prevista para la ejecución de la línea tres del metro bilbao que también se ha cumplido dentro del plan interinstitucional con el fondo para la reactivación económica firmado entre gobierno vasco

en tercer lugar se instaba al gobierno vasco y a la diputación a la firma de un nuevo convenio para la finalización de los trabajos necesarios sin que eso

y como decía la consejera que diese continuidad y garantía de financiación

que ya estaba agotado presupuestariamente y finalmente se instaba también al gobierno y diputación a que estableciesen medidas que paliasen

y en aquel momento también se dijo que se estaban poniendo las medidas oportunas

de todos los grupos de esta cámara a excepción de eh bildu que votó en contra

que se está a punto de firmar el convenio a que se refiere el punto tres de aquella enmienda y a su vez

el dos mil dieciséis es aquí donde eh bildu al igual que hizo posicionándose en contra de la enmienda transada en el pleno del veintitrés de mayo vuelve a intentar que no se cumpla el mandato parlamentario dificultando la firma de dicho convenio y tratando de poner en complicaciones el cumplimiento de lo acordado

apoyar la enmienda bajo el paraguas de no a cualquier precio ni de cualquier manera el desfase presupuestario el modelo de gestión del dinero público la supuesta apuesta por el cemento y las molestias de las obras a los vecinos y vecinas y como esto debe ir por capítulos

alegando temas laborales que se han tratado con posterioridad en esta cámara en los plenos de los meses de octubre y noviembre aspectos estos que no fueron ni siquiera mencionados el pasado veintitrés de mayo al tratar sobre el fondo del asunto

del gobierno estatal que marcaba de febrero que marcaba las pautas de lo que iba a ser la ley de la reforma laboral sinceramente aunque sus palabras dicen otra cosa los hechos

actuaciones o actitudes es entorpecer la labor del gobierno por lo tanto

lo que pretende es dar cumplimiento al mandato parlamentario de veintitrés de mayo y también entendemos que como eh bildu no lo apoyó en aquel momento pues lo dicen claramente en el escrito

al convenio para la continuación de las obras de construcción y financiación de las obras del metro de bilbao porque al final realmente es eso es oponerse a la continuación y finalización de los plazos acordados de las obras del metro de bilbao

dado que el de dos mil ocho estaba agotado se decía que antes del quince de septiembre del dos mil trece se debería proceder a la firma del nuevo convenio

se prorrogarán hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil trece los criterios hasta ahora fijados

y las consecuencias que traerían la no aprobación del convenio y la nueva firma del convenio pondrían

la ejecución del mandato parlamentario al margen de esta valoración de tipo político hemos de decir también que se trata de un convenio como dice el mismo convenio

lógicamente adaptando su redacción a los cambios normativos habidos

que puede incorporar aquellas cuestiones que las partes consideren necesarias siempre que no atenten contra

y también hay que tener en cuenta que es un convenio entre varias instituciones implicadas que no se pueden adoptar

sobre todo para no volver a épocas pasadas que también hicimos referencia en el pleno de veintitrés de mayo por otro lado también mencionar que

a quien por cierto en el convenio de dos mil ocho también correspondía la asunción de la realización de la obra y la contratación dirección e inspección de la ejecución de los proyecto aprobados por el departamento correspondiente del gobierno

creado por el gobierno vasco y que como tal y como poder adjudicador va a cumplir como no puede ser de otra manera la normativa vigente en materia de contratación laboral social medioambiental etcétera de hecho como comentaba la consejera y no lo voy a repetir en todos los pliegos

una cláusula al respecto cláusula que es la misma que rigió y que se recogió en los pliegos tramitados con el anterior gobierno en esas cuatro obras que como hemos dicho se ejecutaron por el gobierno socialista será también las que se recogerán en los pliegos posteriores además también el propio gobierno vasco es el garante de la legalidad laboral es la autoridad laboral

entendemos que el gobierno cuenta con instrumentos suficientes para hacer valer en los contratos que formalice unas condiciones laborales dignas la seguridad y salud laboral y la prevención de riesgos laborales de los trabajadores y trabajadoras que sean empleados y empleadas para la ejecución de la obra o la prestación del servicio contratado

la resolución seis barra dos mil ocho de dos de junio sobre incorporación de criterios sociales ambientales y otras políticas públicas en la contratación de la administración de la comunidad autónoma y de su sector público que ya estaban vigentes también en adjudicaciones del gobierno anterior

una serie de medidas destinadas a paliar los efectos perniciosos de la reforma labora al menos en lo que respecta a la contratación pública

de que la vía puesta en marcha por la diputación foral de gipuzkoa es la adecuada y debe extenderse a todas las obras públicas y a todas las administraciones creemos como decía la señora consejera que hay argumentos para decir todo lo contrario ya que se trata de una propuesta que no es jurídicamente segura ya que dicha norma foral se encuentra recurrida en los tribunales ordinarios de justicia

y por la abogacía del estado por lo tanto y guiándonos por el principio de seguridad jurídica no es nuestra intención la inclusión en los pliegos de cláusulas que nos puedan llevar

judicializada con lo que ello puede suponer de perjuicios para los trabajadores y trabajadoras y para los vecinos y vecinas afectadas no vamos a ser nosotros los que sembremos inseguridad jurídica para los posibles contratantes y sobre todo teniendo en cuenta que esto podría generar nuevamente incertidumbre a los vecinos y vecinas afectadas de txurdinaga de otxarkoaga

nosotros hoy queremos transmitirles tranquilidad ya que vamos a rechazar la oposición de eh bildu

se va a garantizar que antes de que finalice el dos mil dieciséis se puede inaugurar esta nueva línea del metro

compromiso y rigor para finalizar quisiera agradecer al grupo popular y a upyd su posicionamiento serio responsable

estamos de acuerdo en que no a cualquier precio y creo que hemos dado argumentos suficientes para justificar que el gobierno y los gobiernos anteriores en esta materia

y no es que haya normativas digamos milagrosas que

de las condiciones laborales y una mayor seguridad en el desempeño del empleo y lo conocerá usted muy bien señora beitialarrangoitia porque una cosa es la teoría y otra es la práctica por tanto con lo que decía antes bidea pausorik pauso egiten da eta

y muy muy brevemente nosotros hemos votado en contra de la oposición que había mostrado bildu este es un convenio como bien ha dicho el señor zorrilla que nosotros

del metro de bilbao antes de lo que estaba previsto por el gobierno creemos que de introducirse la cláusula que estaba pidiendo bildu

de gipuzkoa está recurrida por la agencia vasca de la competencia y por la abogacía del estado

que es el respeto del convenio territorial creo que está absolutamente respetado que hay otros medios para hacerlo y que de esta forma lo mejor es que el convenio se apruebe porque ya digo
será el instrumento de que la línea tres del metro vea la luz cuanto antes nada más muchas gracias eskerrik asko

en lo que esté en nuestras manos los socialistas vascos no queremos retrasar la construcción de esta importante infraestructura que va a llevar el metro

esperemos que sirva de inspiración para que este gobierno vasco

que se encuentran dormidas en el sueño de los justos con nuestra abstención los socialistas vascos hemos querido permitir que siga adelante la tramitación de este convenio

desde la responsabilidad y desde el servicio al ciudadano nosotros no vamos a hacer lo mismo que hizo el pnv la pasada legislatura con la ampliación del tranvía de vitoria abetxuko

después de que en su momento los responsables de transporte de la diputación foral de álava

un trámite casi de cortesía institucional entre las juntas generales y el parlamento vasco y lo hizo una vez más para entorpecer la labor del lehendakari lópez señor zorrilla ya que usted ha agradecido la actitud coherente de upyd y del partido popular que por cierto que upyd le ha fallado porque se ha abstenido

esa cortesía que tuvo el partido nacionalista vasco con el lehendakari lópez nosotros sin embargo no vamos a actuar como en su momento lo hizo responsablemente el pnv y hemos permitido que el convenio pase este trámite y lo hacemos con la abstención

el grupo parlamentario socialista comparte la alegación realizada por eh bildu de que en las obras públicas se tenga que aplicar el convenio laboral en vigor en el territorio en el que se esté ejecutando las obras

pasado diecisiete de octubre esta cámara debatió una moción consecuencia de interpelación de eh bildu sobre el cumplimiento del convenio laboral territorial en todas las obras públicas de la comunidad autónoma

por la cual el parlamento instaba al gobierno vasco en virtud del artículo ciento catorce punto tres

que en el plazo de dos meses apruebe un pliego de cláusulas administrativas generales en el que se contenga una cláusula que exija el sometimiento a los convenios sectoriales territoriales de todo adjudicatario o subcontratista

y que sancione el incumplimiento de dicha cláusula como causa de resolución del contrato de que se trate hoy dos meses después por cierto hoy ha pasado el plazo que se le dio esta cámara al gobierno así que esperemos que tengan elaborado ya ese pliego de cláusulas administrativas generales

entonces el mismo posicionamiento que tuvimos en la diputación permanente del dieciocho de julio donde se aprobó instar

se valore positivamente el hecho de que las condiciones laborales del personal de las empresas concurrentes

con nuestra abstención acabamos de dar un voto de confianza a este gobierno para posibilitar que el convenio de la línea tres del metro de bilbao sea aprobado y por ello confiamos y esperamos

atendiendo a lo que la mayoría de esta cámara aprobó en su día mandate a ets que en las licitaciones que realice

sectoriales territoriales de los adjudicatarios o subcontratistas no dude que los socialistas continuaremos estando encima de ello y se lo seguiremos exigiendo no vamos a esperar

y encima se presenten como adalides de que la defensa de los derechos de los trabajadores
muchísimas gracias y ya está eskerrik asko zaballos jauna